se repite la tónica del dos mil quince los convenios sectoriales firmados por madrid afectan a más trabajadores y trabajadoras vascas

convenios de ámbito estatal que en algunos casos impiden negociaciones en otros ámbitos sin previa autorización de los firmantes en el estado o impiden que algunas cuestiones se puedan negociar en ámbitos

tenemos claros ejemplos de todo esto entonces

peluquerías tenemos hostelería por ejemplo donde se impide la apertura de nuevos ámbitos de negociación si la comisión paritaria estatal

tenemos conservas que no admite ámbito de negociación inferior al estatal y que ha dejado sin efecto

en este momento podemos hablar del acuerdo marco estatal de atención a las personas dependientes o al primer convenio estatal del metal

pero tiene su importancia y es importante volverlo a decir dicha estatalización de la negociación colectiva está teniendo un impacto mayor

y esto tiene una consecuencia directa en las condiciones de salarios y de condiciones laborales de las mujeres eta gainera

tan solo el veintiocho coma dos por ciento de los trabajadores y trabajadoras tienen reguladas sus condiciones laborales

en araba bizkaia y gipuzkoa mientras el setenta y uno coma ocho por ciento tiene los convenios sin renovar o decaídos

el cincuenta y tres coma tres por ciento según los datos que se dieron a conocer ayer mismo y decaídos

normaltasunez bizi duela hori guztia el presidente de confebask plantea que la rebaja de impuestos se aplique en dos mil diecisiete

cuesta muchos millónes que los funcionarios vascos trabajen treinta y cinco horas

del siglo veinte generan conflictos artificiales lotsagarriak diren

arratsalde on completamente de acuerdo con usted señora arrondo en que el estado de las relaciones laborales en euskadi es en fin horroroso

claro usted ha advertido a tiempo que efectivamente

antes incluso de verlas de que en este debate iba a haber pocas coincidencias

aun partiendo del hecho de que efectivamente el estado de las relaciones laborales

y tiene áreas de mejora importantes pero así como usted lo atribuye a una serie de causas que acaba de explicar para nuestro grupo desde luego nada más lejos algunas de las cuestiones que plantea podían ser atendibles si quienes invocan estas razones tuvieran algún ápice de coherencia pero nosotros entendemos que no

eran las correas de transmisión de los partidos pero veo que ustedes están invirtiendo esa relación y traen aquí justamente las apelaciones de esa mayoría sindical que echa las culpas del estado de las relaciones laborales a todo el mundo

teniendo en cuenta que es justamente el factor diferencial de lo que es la representación sindical en el resto del estado aquí la representación sindical mayoritaria es la que es y justamente tenemos la menor tasa de cobertura de convenios colectivos como usted acaba de decir

una serie de puntos y habla de estatalización de los convenios realmente

o una entidad que realmente puede establecer con autoridad y con rigor cuál es el estado de las relaciones laborales es el consejo de relaciones laborales que por cierto

está hecho además mediante una fuente normativa que tiene rango de ley y justamente este tipo de órganos con rango de ley tienen mejor servicio o más eficacia que otros

también regulan en el ámbito autonómico relaciones laborales bueno pues el consejo de relaciones laborales en su informe sociolaboral del primer trimestre del dos mil dieciséis

desde hace ya varios trimestres el incremento salarial de los convenios vigentes en el conjunto del estado se viene situando por encima del registrado en los convenios de la comunidad autónoma del país vasco así el incremento salarial registrado a finales de marzo de dos mil dieciséis en el conjunto del estado fue del uno coma doce por ciento mientras que el de nuestra comunidad

esto desdice lo que plantea usted de que los convenios de naturaleza estatal

abiertamente por lo tanto ese argumento

se puede manejar se puede decir siempre y cuando no se contraste con los datos

pero los datos lo que dicen es que ahora bien a qué responde que tengamos mayor presencia de los convenios estatales

permanente y de larga data sobre la negociación colectiva esto es sabido y ha habido varios episodios en los que se ha tratado de romper ese bloqueo y eso no ha sido posible precisamente porque la mayoría sindical está en esa tesis que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo

pero lo que no es de recibo es que después de eso se permita plantear que el problema no está en los agentes sociales sino está allende la frontera

que habla del marco vasco de relaciones laborales pues esto es otro tanto

vasco de relaciones laborales bueno pues el consejo de relaciones laborales vasco

de naturaleza bipartita donde tendría lugar el encuentro entre agentes sociales y económicos

óbice alguno para que esté en el consejo económico y social español no en el vasco para que esté en los consejos generales y comisiones ejecutivas de la seguridad social o del instituto social de la marina

y está también en la comisión consultiva nacional de convenios colectivos es decir no tiene ningún problema en estar presente en ámbitos de representación del estado español sin embargo hace el vacio a las instituciones que aquí nos hemos dado hombre eso a nosotros nos parece pues un poco burla un poco insulto

la actividad sindical es en este ámbito de representación y no décimos con eso que ese ámbito de negociación o ese ámbito de debate y de discusión

pero si se invoca la confrontación como gran paradigma de una estrategia sindical

confrontando planteando y estableciendo después realmente cuáles son las discrepancias cuáles son los motivos del desacuerdo

intención de llevar a cabo ningún tipo de diálogo y se menosprecia nada más y nada menos el hecho mismo del diálogo en sí pues es que realmente

no es posible creer nada de todo esto ha habido a lo largo del tiempo señora arrondo y usted lo sabe varios intentos varios episodios para

esta situación con la negociación colectiva y esto no ha sido posible porque efectivamente la fuerza sindical mayoritaria utiliza esa representatividad para bloquear todo eso

que ya que no se pueden hacer convenios de naturaleza estatutaria que tampoco se pueden hacer los de eficacia limitada es decir impidiendo que otros puedan llevar a cabo

también en el ejercicio de su libertad sindical luego

que las relaciones laborales acordes con nuestro modelo de producción nuestra realidad en consecuencia en relación nuevo estatus a negociar mire

tiene presentadas propuestas concretas recientemente tiene presentadas unas propuestas sobre la negociación colectiva y las relaciones laborales de euskadi

pero esto sí constituye al menos una propuesta clara para desbloquear la negociación colectiva y para activar las relaciones laborales y mejorar su estado cuando nosotros como grupo parlamentario veamos claramente

hacen propuestas y hacen aportaciones concretas de cómo desbloquear esto más allá de las proclamas y más allá denostar lo que ocurre más abajo

pues es que eso nos parece básicamente pues en fin costumbrismo folclorismo

lo importante es la defensa de los derechos de los trabajadores y como resultado no se puede decir que la mayoría sindical en euskadi en el país vasco esté dando

están muy por debajo de lo que sería la media española pero todavía hay más datos que son bastante elocuentes

los convenios que llega a firma ela dan cobertura

que la representación sindical que tiene como sindicato cosa que no les pasa a los demás sindicatos que los convenios que firman dan tasas de coberturas superiores a la representatividad sindical

de ahí podemos deducir claramente que esa postura que es lícita es legítima por supuesto pero no da lugar ni mucho menos a reprochar al resto del mundo que el estado de cosas que el estado de la situación el estado de las relaciones laborales la falta de negociación colectiva porque

preferencia aplicativa a los convenios sectoriales territoriales y eso se ha dicho por parte de los sindicatos que no conforman la mayoría sindical

por qué porque es que curiosamente y coincidentemente

que los convenios de empresa eran justamente el objetivo central de esa reforma laboral del gobierno español

de tal grado de inconsistencia e incoherencia sus razones tendrán para hacerlo pero es que no es admisible para nosotros desde luego comprar ese tipo de

falta lo principal es coherencia con los actos propios si realmente hay voluntad de mejorar las relaciones laborales y de mejorar la negociación colectiva
eso se demuestra andando eskerrik asko itxaso jauna

hitzarmen sektorialen gainetik como bien sabe estamos en contra de la última reforma laboral lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y pueden contar con este grupo

darle la vuelta a la situación para trabajar y dejar sin efecto la misma es también una realidad incuestionable que muchos convenios colectivos llevan

con anterioridad a la última reforma laboral ha sido la estrategia seguida por alguno de los sindicatos con mayor representación en euskadi asimismo

empresa primando los mismos por encima de los sectoriales como también bien

es una estrategia que no compartimos pero que ha sido avalada por ela durante mucho tiempo y como dice el refrán de aquellos polvos estos lodos ahora que la reforma laboral ha desequilibrado la relación de fuerzas entre la patronal y los y las trabajadoras los sindicatos

se ven en una situación precaria donde su poder se ha visto

iniciado una campaña contra la estatalización de los convenios colectivos pretendiendo el apoyo de las instituciones vascas y como muestra

presentada por eh bildu que hace suyas la mayoría de reivindicaciones de ela interpelazioan esan zenuen behar beharrezkoa dela instituzio publikoetatik

en general las condiciones laborales de los y las trabajadoras de euskadi pero por qué no se han firmado o actualizado tantos y tantos convenios colectivos sectoriales cuántos trabajadores y trabajadoras de euskadi no tienen la cobertura de un convenio colectivo algo de responsabilidad tendrán tanto los representantes empresariales

parece que se nos olvida que los titulares de las relaciones laborales son los representantes empresariales y los de los trabajadores esa responsabilidad es de ellos y si el gobierno entrara en ese terreno sería criticado por injerencia por lo tanto un poco de seriedad el segundo punto de la moción pide al gobierno proactiva que ya se da a nuestro juicio la viceconsejería de empleo la inspección de trabajo y el consejo de relaciones laborales realizan un notable esfuerzo

que esa es su labor y apoyo a la negociación y resolución de conflictos están continuamente dispuestos a promover y a apoyar acuerdos negociales siempre a solicitud de alguna de las partes lo contrario

ajenos a las relaciones laborales desvirtúa los sistemas de autonomía colectiva eusko jaurlaritzak gizarte eragileei

todos os asuntos que usted menciona en su iniciativa señora arrondo mesa en la que los sindicatos abertzales mayoritarios han decidido

legítimo sí irresponsable también

y no hacer nada mantener una actitud totalmente pasiva respecto a las competencias propias diálogo consenso acuerdo firma de convenios asimismo nos parece importante señalar la labor fundamental que tienen los representantes sindicales en el mantenimiento

la de unos sindicatos evidentemente mayor que la de otros que pudieran tener también en su destrucción el tercer punto de la iniciativa es un brindis al sol un deseo

pero díganos cómo se lleva a la práctica respetando la legalidad vigente y en cuanto a la mesa de diálogo social que era el fundamento de la enmienda del partido socialista nos parecía bien lo que proponían

en la nuestra a la que se ha añadido la de los socialistas con la coletilla de respetar siempre también las competencias del consejo de relaciones laborales que a nuestro juicio también

gracias señora presidenta buenas tardes a todos

la moción de las medidas a adoptar por el gobierno ante el estado de las relaciones laborales en euskadi yo creo que señora arrondo

usted es libre de preguntar al gobierno también debiera dirigir la mirada en algunos casos

afuera de este parlamento y afuera del gobierno vasco sobre qué medidas se pueden adoptar para mejorar las relaciones laborales en euskadi y sin duda

propone en primer lugar la iniciativa el rechazo a la estatalización de los convenios laborales una materialización del marco vasco de relaciones laborales y por último que ese marco y solo ese marco constituye la herramienta para la consecución de una sociedad más justa y cohesionada

sea plena la moción como usted ha dicho trae causa de la interpelación relativa sobre que debe hacer este gobierno para favorecer la negociación colectiva en nuestra comunidad

qué pueden hacer otros qué pueden hacer otros y bastante más efectivo que lo que puede hacer este gobierno porque nuestro grupo está de acuerdo en algo que dijo el consejero en que la raíz en la negociación colectiva está en la voluntad de dos partes confrontadas

son estos los que tienen que contraponer sus intereses y llegar a un acuerdo a un pacto pero como ha dicho el señor itxaso para eso hay que confrontar para confrontar hay que sentarse

fomentar efectivamente esa negociación y realizar trabajos de intermediación pero no sustituirla porque además

porque eso genera confianza y esa confianza trae consigo un aumento de la competitividad que es bueno

para el crecimiento económico y por ende para el empleo hablan como decía

parece que la estatalización es absolutamente perniciosa ya le ha dicho el señor itxaso que en algunos casos

y vuelven cómo no a poner como causa de ello a la reforma laboral y no lo hace usted sola señora arrondo también es cierto que el señor toña lo hizo

siempre es bienvenido usted hoy aquí y la señora la portavoz del partido nacionalista vasco también ha hablado de las dos reformas laborales sin embargo el señor toña no el señor toña se le olvidó mencionar

reforma laboral en la que el partido nacionalista vasco se abstuvo y que fue gracias a esa abstención como salió adelante y que influye claramente es verdad en la estructura de la negociación colectiva mediante la modificación del artículo

luego hay que decir que hay que ir más allá de la reforma del dos mil doce pero hay que ir más allá

porque no son estas las causas de la dificultad de la negociación colectiva en euskadi los problemas de la negociación colectiva en euskadi vienen de lejos

como causa exclusiva las reformas laborales no mientan no es así y no lo hemos dicho desde el partido popular ni tan siquiera lo ha dicho el gobierno de madrid no han sido las propias centrales sindicales las que han hecho esta afirmación

han podido agravar el problema de la negociación colectiva en euskadi pero que vienen de atrás los problemas por el sistemático bloqueo de la negociación

de baja cobertura de convenios esto lo pone de manifiesto un sindicato nada sospechoso

con el partido popular que es comisiones obreras de euskadi en la presentación de un documento en el que hace balance de la evolución de la negociación colectiva desde los años dos mil dos dos mil catorce destacaba usted señora arrondo en la interpelación que el marco de negociación colectiva estatal está por encima del marco autonómico y que euskadi ha cedido protagonismo en la negociación en los convenios de madrid

una preocupación ahora de algunos sindicatos sin embargo es mirada con escepticismo por otros sindicatos que lo que dicen es que ojalá esa preocupación hubiera surgido antes porque es verdad que hasta el año dos mil diez la prevalencia de los convenios de ámbito provincial y autonómico sobre las

a partir del año dos mil diez a partir de esa reforma es necesario suscribir acuerdos intersectoriales o sectoriales o convenios de comunidad autónoma

entre convenios de distintos ámbitos es decir señora arrondo

a partir del dos mil diez se puede mantener la prevalencia de los convenios de comunidad autónoma que estos afectaran a lo regulado en el ámbito estatal siempre que sea acordado por mayoría pero para ello para ello es necesario algo más que criticar y que estar en la pancarta es necesario sentarse a negociar y algunos sindicatos eso no lo han hecho

algunos que ahora se muestran muy preocupados no han participado en las negociaciones que pudieran haber impedido eso

el comercio tiene blindada la negociación colectiva sectorial en euskadi y por eso sindicatos como comisiones obreras se preguntan lo que vale para el comercio por qué no vale para otros sectores también este sindicato ha señalado que no es incompatible la negociación colectiva sectorial

la situación de bloqueo actual y partiendo de la defensa del convenio sectorial territorial se convine con la negociación del ámbito de empresa

que ha señalado el señor itxaso con relación a la estructura de la negociación colectiva y la concurrencia de convenios colectivos señalan

la preferencia aplicativa de los convenios territoriales e interterritoriales suscritos en euskadi que estén vigentes sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo marco de ámbito estatal preexistente o posterior a la firma de un posible acuerdo luego parece señora arrondo

otra cosa es que algunos no quieran utilizar esas herramientas porque claro estar en la pancarta siempre es más cómodo que sentarse a negociar parece ser proponen en segundo lugar un clásico también la consecución de un marco propio laborales que también hemos debatido más veces en esta cámara porque ha habido mociones anteriores demandando este mismo compromiso y yo le pregunto señora arrondo un marco vasco para qué para luego no acudir para luego decir como con la mesa de diálogo social que previamente hay que analizar el modelo socio económico

no se pueden celebrar reuniones de la mesa de diálogo social porque además si algunos no van tampoco quieren quieren que se rompa la baraja que no haya reuniones además

ese marco propio esa sustitución del modelo socio económico es la panacea solucionadora de todos los problemas cuando se han podido tener ámbitos propios de actuación algunos sindicatos no los han querido y le voy a poner un ejemplo

la ley establecía que ante la falta de acuerdo entre las partes estaba previsto un órgano que pudiera dar soluciones a discrepancia

era la comisión consultiva nacional de convenios colectivos para aquellos centros de trabajo de empresas situados en el territorio de más de una comunidad autónoma y en los demás casos se recurría a los

no querían no querían y lo dilataron y es más finalmente este órgano conocido como orpricce se creó pero sin la participación por ejemplo

se aprovechó se aprovecha cómo no para escribir la carta a los reyes magos y solicitar el nuevo estatus parece que ya no le llaman independencia ya impera la nomenclatura eufemística del partido nacionalista vasco verdad y también ustedes hablan de nuevo estatus y reclaman competencia plena en materia laboral

el ejercicio pleno de esa competencia es antes o después de cambiar el modelo socio económico en fin nosotros no hemos propuesto ninguna enmienda a su moción porque creemos que más allá de la denuncia más allá de la pancarta existen medios para conseguir lo que se propone desde luego en cuanto a la estatalización porque con relación al marco propio de relaciones laborales lo hemos debatido en otras ocasiones qué es

una aseveración absolutamente maximalista que solo habrá una sociedad justa y cohesionada si todo

sino no permítanme que no esté de acuerdo eskerrik asko llanos andera erantzunen txandara pasatuz arrondo anderea zurea da hitza

iba a ser difícil acordar algo con el partido socialista en relación

pero de ahí a que cuando eh bildu trae una propuesta usted nuevamente se dedique a criticar en vez de responder a eh bildu a responder a un sindicato

lo que eh bildu ha traído aquí hoy es una propuesta que defiende eh bildu y que es coincidente con la mayoría sindical de este país el problema

en otro marco desde mi punto de vista pero no respondiéndole a eh bildu como si fuese

otra cosa en cualquier caso no sé a quién estaremos representando para algunos y para algunas también

ha hecho mención a lo mismo quizá ustedes tanto la representante del partido nacionalista vasco y del partido socialista se deberían de preguntar a quiénes están defendiendo

y ustedes a quiénes están defendiendo zeren

y del nuevo estatus las condiciones laborales son también nuevo estatus lo que hoy estamos debatiendo aquí es un nuevo estatus y un nuevo estatus

se hace las relaciones laborales es hablar de un nuevo estatus

tienen que influir en las relaciones laborales

catedrática de ética y filosofía política de la universidad de valencia que estuvo unas jornadas de cáritas en bizkaia en relación al papel que tienen las instituciones en la regulación de la relaciones

laboral es interesante eta laburtuz eta amaituz

pues nosotros señora arrondo con franqueza le diré que creemos que a pesar de que efectivamente

perturbaciones y posibles invasiones competenciales y este tipo de cosas en este asunto creemos y estamos convencidos y los hechos a nosotros nos confirman que es un problema diferente es una auténtica dejación de las funciones

no solo no lo ejercen sino que además dicen que si ellos no están nadie más puede llevas adelante

saber que esa mayoría sindical sí participa en la negociación del convenio colectivo de puertos del estado pero esa misma pasión que pone en esa negociación que es de alcance estatal por qué no la pone en nuestro ámbito para otras cosas yo he sido desde luego muy insistente

para nada pero pensamos que es un ámbito de encuentro precisamente para que todas esas discrepancias todas esas diferencias que separan al capital del trabajo

para que luego las diferentes mesas sectoriales puedan llevar a cabo negociaciones con más posibilidades de éxito porque pensamos que efectivamente el diálogo social no puede ser un término

era el toten de todo un sector importante de la sociedad si tan importante era entonces el diálogo apelando otras cuestiones por qué no puede serlo en materia laboral por qué ahora el diálogo es algo

cuando además el problema es que ni siquiera hay alternativas porque la alternativa señora arrondo usted dice a quien defendemos nosotros con mejor o peor éxito defendemos trabajadores y cuando

que la representación de los trabajadores invocando la misma arroja como resultado una tasa de cobertura muy por debajo de lo que es la media estatal

inquietante porque eso de presumir de una serie de cosas

alegatos grandes proclamas pero luego el resultado es el que es

el estado de las relaciones laborales en fin es bastante malo y

pero es que las relaciones laborales donde se tratan

y vemos que la negociación colectiva pues efectivamente está como esta por todo lo que hemos dicho pero verá yo creo que hay un sentimiento compartido incluido también la patronal de que a lo mejor es momento de repensar la cuestión de las relaciones laborales en el ámbito vasco

la mayoría sindical está en esa tesitura de repensar junto con el resto de fuerzas y de instituciones y de organizaciones y tratar de ver por dónde pueden buscarse nuevos modelos de relaciones laborales por supuesto

coincidencias lógicamente porque los intereses que enfrentan al capital y al trabajo ya sabemos

pero es que precisamente para eso se crean esos órganos de encuentro para ir dirimiendo las diferencias para ir

a mejorar de forma constatable de forma evidente que mejoran las condiciones que mejoran las condiciones de los trabajadores y que por extensión mejoran el conjunto de la economía y de la sociedad mejoran sus condiciones de trabajo mejora la demanda interna en fin hay más paz social hay un sinfín de ventajas

sean no digo pacíficas porque no lo van a ser nunca pero que estén basadas por lo menos en ciertos consensos en cierta capacidad para integrar voluntades para eso son los consejos de relaciones laborales porque ese marco que ustedes plantean

que perfectamente pueden acotar nuestro ámbito vasco de decisión en materia laboral y hay fuerzas sindicales

ortuzar hablaba del nuevo estatus y que las condiciones laborales también son nuevo estatus

que se reúnan para hablar con él pero es que su representante anterior dijo que es que no iban a participar de esa escenificación

bien señora arrondo la verdad es que creo que no voy a agotar mi tiempo porque casi todo lo ha dicho y porque usted a mí no se ha limitado

ustedes como en tantas otras ocasiones reparten carnets de quién tiene representación y quién no

nos han dicho que éramos residuales

en la que se decidía quién podía hacer política en este país y quién no

algunos no podíamos hacer política en este país

lo que usted ha dicho hoy aquí que somos residuales y que realmente ni me iba a contestar usted ya le digo parece que reparte

ustedes tienen la representación de los vascos solo ustedes la representación de los trabajadores solo ustedes

los que ustedes dicen representan a los trabajadores otros no

de quién defiende a los vascos de quién defiende a los trabajadores y todo lo que no sea ese label que ustedes dan

pues no vale porque ustedes hacen con determinados sindicatos sobre todo con uno al que tienen de referencia un intercambio de posiciones ustedes hacen la labor sindical incluso la institucionalizan en este parlamento y los otros se dedican a hacer política

hacer política interconectados interconectados y cambiando sus papeles y mientras tanto los trabajadores sin convenio porque

los trabajadores vascos con esos convenios estatales satanizados por ustedes porque determinados sindicatos que tendrán mucha representación y el label

déjame que le explique no se quieren sentar a negociar porque prefieren estar en la pancarta porque prefieren hacer política y difícil es llegar a un acuerdo

se sienta pero no es que no se siente es que pretende que no se siente nadie porque esto es como lo del niño y el balón como yo no juego me llevo la pelota pues ustedes pretenden hacer lo mismo es como yo no quiero ir aquí no juega nadie

de mirar eso sí que es común al nacionalismo mirar siempre a madrid y en lo suyo mirar al resto a todo lo que se tiene alrededor

todo el mundo es culpable salvo ustedes mismos no

lo que le digo es que interpele usted a esos sindicatos

que interpelen a esos sindicatos le digan que se sienten a negociar

que esas satanizadas reformas permitiendo precisamente para evitar como usted dice ese mal

tienen que sentarse a negociar mesedez isiltasuna para eso tienen que dejar los maximalismos y para eso tienen que respetar a los demás

son los que están en posesión de la verdad todos los demás

sí muchas gracias señora presidenta arratsalde on denoi señorías todo sistema público necesita una evaluación

propuestas de mejora incluso los proyectos de promoción de la salud prevención de la enfermedad y diagnóstico precoz de hecho todos ellos

compárese los proyectos de vacunas de hace veinte años a los de hoy no se parecen en nada ni el calendario ni el tipo de vacuna ni el medio en el que se

al cabo del tiempo precisa evaluación y naturalmente aunque vaya muy bien permite programas y proyectos de mejora por tanto

el programa de detección de cáncer de mama funciona bien consigue un ochenta por ciento de

deciden no estando enfermas acudir a una revisión es decir que la participación de la población a un proyecto a un programa

precoz de una enfermedad requiere voluntariedad por parte de la población requiere también concienciación de esta población pero por parte de la administración una gran facilitación de esos programas nosotros el grupo socialista no traemos por traer iniciativas

las que traemos ahora es porque nos han trasladado desde la población dificultades de acceso a estos programas de

por ejemplo mujeres que acceden desde la rioja alavesa que tienen ciento cincuenta kilómetros de ida y vuelta con todos los incidentes que se pueden presentar en cualquier servicio al que se acude por ejemplo vienen de la rioja alavesa

la población diana que participa en este programa son mujeres de cincuenta a sesenta y nueve años no es un gran porcentaje de mujeres mayoritariamente conductoras

o vienen en autobús coste y tiempo para acceder al programa

qué duda cabe con que el equipo está estropeado hay problemas técnicos falta el médico

después de haber perdido una mañana de trabajo o en el cuidados a otras personas también es un

lo cual desincentiva enormemente la participación en este programa no solo de ese año sino para futuros años porque todos sabemos que cuando un programa voluntario de participación estando en buen estado de salud

es muy fácil fallar los siguientes por tanto queremos creer queremos que el apoyo a este programa

no se queden en ochenta sino que se llegue al cien por ciento de acceso a las personas y por lo tanto

esta propuesta que planteamos es más efectiva que proponer que se pongan servicios de radiología

y de acceso ilimitado y cercano al domicilio porque quienes creemos en la sostenibilidad del sistema sanitario público defendemos una organización racional que busque las mejores soluciones no solo a corto plazo sino también

y esfuerzos organizativos que no sean proporcionales al grupo de población al que van dirigido

no queremos que ninguna mujer que pueda evitar ser diagnosticada en fase tardía y por lo tanto con gran coste personal en su vida y sufrimientos pueda ser diagnosticada tarde en vez de ser diagnosticada tempranamente que significa muchos menos sufrimientos servicios y tratamientos mucho de menor intensidad pero es que además son infinitamente más sostenibles para el sistema sanitario porque cuando un diagnóstico de cáncer se efectúa tardíamente

el pronóstico suele ser fatal mientras que como se ha visto con el cáncer de mama cada vez que el diagnóstico se hace en fase temprana los éxitos son cada vez mayores por tanto y por otro lado la fórmula que planteamos

de todo signo político cuentan ya desde hace varios años con estas unidades móviles para las mamografías por ejemplo navarra la rioja castilla león

o con una mayor dispersión geográfica que euskadi pero también sé que hemos sido pioneros en lograr objetivos y aquí lo que nos proponemos como objetivo como digo es llegar

como decía antes es cuestión de sostenibilidad para el sistema sanitario

no solo económico sino también es ofrecer equidad para el colectivo al que va destinado el programa porque si la persona que vive en la rioja alavesa no tiene acceso al programa como tiene la que vive en vitoria eso no es equitativo

que la margen izquierda que eibar que tiene que ir hasta donosti ciento cincuenta kilómetros

es ahorro en tiempo para las mujeres es ahorro en el desarrollo del cáncer

naturalmente que significa un desembolso ahora pero es un enorme ahorro futuro

pero como todos los programas de prevención requieren una inversión requieren un gasto es decir las vacunas tienen un costo importante pero todos

necesario efectuar un esfuerzo en compra de vacunas que evitan

y de ingresos posiblemente ingresos hospitalarios o el diagnóstico precoz de cáncer de colón también requiere una inversión pero fíjense ustedes qué ahorro sanitario hay en materia de tratamientos posteriores no solo quirúrgicos uso de quirófanos ingresos hospitalarios radioterapias en fin otros programas como el padi que son también de prevención

en contratos con médicos que hacen este servicio pero de nuevo volvemos a que se mejora enormemente la salud de nuestra población que es nuestra obligación como poderes públicos y suponen además grandes ventajas sanitarias y de calidad de vida

en ingresos hospitalarios tratamientos farmacológicos que exigen a su vez

especializado y equipo todos estos programas de diagnóstico precoz

y participación voluntaria de una población no enferma qué debe ofrecer el gobierno a cambio para facilitar la adhesión pues debe ofrecer accesibilidad y gratuidad por eso nos extraña esa actitud defensiva del grupo que apoya al gobierno con su habitual que sigan haciendo

no permite la mejora en la adhesión a los programas ahí tenemos el programa

con un sesenta y pocos por ciento de adhesión al programa

pues no nos llega la información desde luego pero no será mi grupo que con tanta razones para criticar al departamento de salud que no busque como décimos

que sea totalmente eficaz y que cubra las lagunas que quedan y esta es una vía sí que estamos cerca de que este parlamento cierre sus puertas

lo que le pedimos es que vaya planificando la adquisición del vehículo del equipamiento técnico del personal sanitario y que planifique de la distribución femenina de entre cincuenta y sesenta y nueve años a la que va dirigido este servicio de forma que el próximo departamento de salud pueda implementarlo de manera inmediata creemos que este programa

funcionamiento permite mejoras y eso es lo que planteamos en diferentes localidades los socialistas porque existe la demanda social

entre el partido socialista proponente de la iniciativa y el partido de eh bildu que últimamente llegan a muchos acuerdos y especialmente en materia sanitaria

a un acuerdo un tanto sorprendente porque si leemos con detenimiento los distintos puntos llegan a pedir una cosa y hasta la contraria

en él efectivamente el cáncer de mama es uno de los tumores malignos más frecuentes

de ahí la importancia de la detección precoz un diagnóstico temprano es una

actuar en las fases iniciales mejorar la calidad de vida y evitar acudir a una cirugía radical tanto es así que este grupo y algunas parlamentarias porque fueron las que llevaron el debate

roncal también cómo este grupo ha presentado a lo largo de las legislaturas anteriores numerosas iniciativas para ampliar este programa

y extenderlo hasta las mujeres a partir de los cuarenta y cinco años

en álava y en el alto deba y luego en el año mil novecientos noventa y siete se extendió al resto de la capv llega desde los cincuenta hasta los sesenta y cuatro años

pero también tengo que decir que con el gobierno socialista fue posible

si no a las mujeres hasta los cuarenta y cinco años en la cobertura de esa franja desde los cuarenta y cinco a los

incluir la ampliación a partir de los cuarenta años es decir de los cuarenta a los cuarenta y nueve años a aquellas mujeres que tuvieron antecedentes familiares con cáncer de mama esto fue posible en el dos mil once siendo consejero el señor

como decía el objetivo es detectar posibles cánceres de mama en el estadio más precoz posible con el fin

por dicha causa y mejorar la calidad de vida de las afectadas y efectivamente señora roncal uno de los objetivos del programa es

dentro de los programas de detección precoz que tenemos de las más elevadas llegando a cifras que sobrepasan el ochenta por ciento mucho más altas que como usted ha señalado aquí el plan

diagnóstico del cáncer colorrectal el procedimiento es que a las mujeres se las cita que entran en el programa en esa franja de edad sin perjuicio de la ampliación de las mujeres con antecedentes se les cita una vez cada dos años

y cuando el resultado en su lectura no es concluyente que esto a veces pasa se vuelve a citar a las mujeres en las distintas unidades de detección para realizar pruebas complementarias

o bien también ecografías las dos o una de ellas si fuese necesario cuando incluso se sospecha que hay un tumor maligno

ese proceso diagnóstico o incluso ya entrar en la fase terapéutica incluso cabe la posibilidad de que

ese estudio para realizar otras pruebas como decía ecografías o mamografías para nosotros el objetivo debe ser aumentar la participación del programa que es uno de los más altos pero sí que es cierto que no nos podemos dar por satisfechos

que se analicen las causas de por qué hay mujeres que no acuden al mismo hay mujeres que porque

o tienen dificultades de acceso que es otra de las cuestiones que en nuestra enmienda hemos planteado que se analice o hay mujeres como todos sabemos que incluso van a la sanidad privada a realizarse

creemos que hay que analizar esas causas por las que las mujeres no acuden al mismo y efectivamente garantizar la accesibilidad

con sus peculiaridades y las peculiaridades propias de cada territorio es lo mejor para garantizar el acceso en equidad o la igualdad en el acceso en este caso

se realice y se analicen esas dificultades de acceso de las mujeres especialmente de la zona rural que son las que como ha quedado claramente también reflejado en la intervención de la señora roncal son las que tienen dificultades

zonas de los tres territorios porque no es lo mismo en álava la zona de la rioja alavesa que la zona de la llanada que la zona de la montaña

y en gipuzkoa por lo tanto igual cada zona puede requerir una solución también específica

efectivamente señora roncal hay unidades en comunidades vecinas pero hay que recordar que estas unidades

jarraitu eskerrik asko que estas unidades se pusieron en marcha y fruto de un estudio y teniendo en cuenta
geográfica de estas dos comunidades autónomas la comunidad foral de navarra y la comunidad de la rioja que hay menos centros de referencia y se pusieron

desde el inicio del programa en los dos lugares es decir no estaba el programa puesto en marcha como aquí y por cierto el programa es de fechas anteriores porque el de la rioja es de mil novecientos noventa y dos

y por lo tanto ahí se consideró y como consecuencia de estudios complementar esa atención con unidades móviles yo he hablado con ellos y es desde luego lo que me han dicho y me han dicho que estas soluciones siempre tienen que venir de un estudio y ellos lo hicieron en su momento y parece oportuno que si nosotros

una solución de estas características bueno pues si ahora ustedes consideran que es el momento lo que considero también nosotros consideramos razonable que se llegue

estudio si hace falta esa solución que no décimos que no pero que venga de un estudio riguroso y sobre todo para garantizar como decía usted la sostenibilidad del sistema

hemos llegado a una enmienda de transacción con el partido nacionalista vasco que recoge fundamentalmente nuestras

al programa nuevas acciones de sensibilización para una mayor participación y que se analice especialmente las dificultades de acceso a la zona rural para implementar medidas y entre ellas

se analice y que se diga que sí o si no pero fruto de un estudio señora roncal no fruto de una ocurrencia

han planteado una cantidad para esta unidad móvil y ustedes cuando gobernaron no plantearon esta unidad y voy acabando señora presidenta pero sí que me gustaría detenerme en la enmienda de transacción

una unidad móvil de mamografías pero de forma transitoria hasta que se implanten medidas estructurales o sea que ustedes son casi menos ambiciosos que nosotros porque nosotros al final décimos que si hay que implantar

que se implante pero fruto de un estudio pero es que ustedes dicen que se implante una unidad móvil de mamografías para acercar el servicio

en los diferentes hospitales o sea que es algo transitorio estamos hablando también

que hacer un estudio es conveniente si son las cifras también que me han proporcionado los que ya tienen experiencia y tienen unidades móviles señora roncal

tener las cifras encima de la mesa y por otra parte en el tercer párrafo hablan que es la iniciativa original de eh bildu voy acabando señora presidenta de que realicen un estudio para implantar un servicio de mamografías

pero el estudio para la unidad móvil no vale y encima ustedes con su acuerdo rebajan su iniciativa original que esa unidad móvil sea transitoria hasta que se adopten medidas estructurales

ustedes que también fueron defensores como nosotros del convenio suscrito por la rioja pues igual a las mujeres de la rioja hay que plantearlas que se puede ampliar ese convenio para que puedan ir

a realizarse determinadas cuestiones en el ámbito sanitario es decir por qué un estudio para plantearnos implantar una unidad de mamografías en el hospital de leza y por qué no plantearnos un estudio que es lo que hicieron las demás comunidades por qué
en unos caso sí y en otros no señora roncal eskerrik asko garrido anderea

población alejada de los centros hospitalarios hori ez da oso

acercar vivimos en un territorio en el que somos dos millónes y poco más de personas en el que estamos usted misma lo ha dicho señora roncal hablando de ciento cincuenta kilómetros de ida y vuelta

en los programas de prevención pero bueno desde luego nosotros lo que nos gustaría es conocer o tener datos sobre cuáles son las verdaderas razones

este tipo de medidas comparativamente hemos dicho que

y ahí la participación es del setenta por ciento setenta por ciento

que al que se refiere entonces las razones pueden ser varias las razones pueden ser varias pero no las conocemos entonces nosotros lo que entendemos es que a la hora de

una base científica por lo menos

sí gracias presidenta buenas tardes la señora roncal nos recuerda la justificación de su iniciativa que el programa de detección precoz del cáncer de mama

en marcha en noviembre de mil novecientos noventa y cinco en álava y en el alto deba siendo una actividad pionera que en mil novecientos noventa y siete efectivamente se extendió

señala que somos conscientes dice los socialistas del amplio margen de personas que a pesar de encontrarse en principio en buen estado de salud acceden voluntariamente a dicho plan pero añade que cuando encuentran dificultades para su acceso abandonan fácilmente su participación

su participación señala que la oferta de detección precoz del cáncer de mama se efectúa generalmente desde unidades hospitalarias a veces alejadas de las zonas rurales

desincentiva a esta población su participación en el citado programa

para facilitar la adhesión de la población a este programa señala que deberíamos acercarles el servicio a la que se dirige y plantea una propuesta concreta que ha sido asumida también por el grupo eh bildu que es la implantación de una unidad móvil de mamografías nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta entendemos que no está lo suficientemente

entendemos que la reivindicación tiene buena voluntad pero no estamos de acuerdo con la solución que se propone una cosa es señalar que efectivamente el servicio puede mejorarse

en la solución que se plantea nosotros no estamos de acuerdo con la solución que se plantea no está suficientemente justificada no se han planteado suficientes argumentos y por esto nosotros yo mismo votaré a favor de la transaccional finalmente firmada entre el grupo popular y el grupo nacionalistas vascos

en el caso de eh bildu y el grupo socialista una solución pensamos errónea o precipitada para mejorar un determinado servicio que en general además

acudan a él lo que se viene haciendo incluso para prestar un mejor servicio y hacer que ninguna mujer pueda quedar fuera

a las mujeres de las comarcas más alejadas en bloque de tal forma que las propias mujeres de los pueblos se puedan organizar para ir varias juntas a las pruebas se hace además siempre

de transporte público si no acuden a la primera cita se les vuelve a convocar a una segunda cita a los tres o cuatro meses incluso por lo tanto se plantea también esta solución es cierto que quien vive a cincuenta kilómetros de vitoria tiene más

que quien vive en la capital pero en general pensamos que quien tiene interés hace todo lo posible

que evidentemente también hay casos se trata de facilitar el acceso en la medida de lo posible facilitar o asegurar y ya digo que el servicio que puede mejorarse funciona bien y las tasas de participación como se ha señalado son elevadas no compartimos lo que proponen

y eh bildu señalaba la señora roncal que no nos sacamos de la manga esta propuesta yo creo que está bien que ustedes señalen

pero creo que la solución que ustedes plantean digamos que no se ajusta a lo que una mayoría de ciudadanos puede pedir y por lo tanto

pensamos que no se acierta en la solución diseñada obviamente hay que facilitar que las mujeres

por qué no acuden y qué dificultades existen que es algo que está recogido en la transaccional

por otro lado somos una comunidad autónoma bastante pequeña como para implementar pensamos este tipo

en otras regiones como castilla y león o andalucía donde hay gente que el hospital más cercano lo tiene a decenas y decenas de kilómetros y los trasportes públicos son muy deficitarios en el caso

que no es una solución razonable señalaba también la señora roncal que hemos sido pioneros en lograr objetivos y estamos de acuerdo esto es cierto pero no estamos de acuerdo ya digo con la solución concreta

y con la transaccional firmada con eh bildu desde luego no se trata de escatimar presupuesto ni servicios sino de acertar con las decisiones que se toman y creo que la transaccional firmada por el grupo popular y el grupo nacionalistas vascos en la buena dirección plantea la realización de un estudio analizar las causas por la que un determinado porcentaje de la población del programa no acude al mismo analizar también las dificultades existentes y poner

deja abierta la posibilidad de implantar una unidad móvil para realizar las mamografías con lo cual yo creo que esta transaccional que ha firmado esos grupos

y votada por una mayoría de grupos por otro lado sí que es cierto que la realización de este estudio podría haber surgido a iniciativa del propio gobierno vasco sin que nadie se lo pidiera pero en fin ya sabemos que este gobierno

que este debate que ustedes han planteado va a servir para que el gobierno vasco realice ese estudio y se pongan las medidas adecuadas para mejorar ese servicio gracias

gracias presidenta señorías agradezco a todos sus portavoces a todos los portavoces de esta

en la que han planteado su opinión y algunas cosas pues permítame que les diga a la señora garrido le preguntaría si cree usted que la población de la rioja alavesa

a hacerse esta participación en el programa de prevención precoz

y qué hace con la población de eibar o con la muskiz porque ocurre en toda la comunidad

comparar la adhesión que tiene el programa de detección precoz de cáncer de colón

porque si mira usted el éxito del cáncer de colón que en cinco años ha llegado al sesenta por ciento pues en el de mama que llevamos veinte años y hemos llegado al veinte

a este programa perdone veinte años de rodaje cuando se supone que con campañas de sensibilización con campañas

en cinco años está en el sesenta creo que hay un apoyo muy diferente

si fuera sincero y no me refiero a su opinión personal sino a las opiniones del gobierno porque mire usted con el banco de leche llevamos dos años y medio haciendo un estudio cada vez que le preguntamos al consejero

para poner en marcha un acuerdo parlamentario de implante de un banco de leche nos dice que lo está estudiando oiga es que si usted le dice que haga un estudio para

ya sabemos lo que es este consejero y luego por otro lado

de la rioja han traído un acuerdo y que eso pues es poca cosa pero mire le voy a decir una cosa en erandio ha habido mil cuatrocientos firmas para no acudir

y eso ha bastado para que el consejero diga que se queden en erandio y que vayan a cruces es decir mil cuatrocientos firmas de erandio

porque las mil cuatrocientos firmas de erandio han sido atendidas por qué no son las mil quinientos de la rioja alavesa vuelvo a decirle que yo

pero detrás de eso hay una falta de credibilidad del departamento que no nos hace ser en absoluto optimistas con la realización de un estudio nada más y muchas gracias

que hay que estudiar las distintas posibilidades y las dificultades de acceso que tienen las zonas rurales de la comunidad autónoma del país vasco y son muy distintas

tampoco nos cerramos para nada a una unidad móvil pero queremos que venga fruto de un estudio como lo fue en navarra y en la rioja

y complementan el programa de detección precoz por cierto que se pusieron desde el principio en el año noventa noventa y dos pero desde el principio y fruto de un estudio

hablado con los responsables de la rioja con los que en su momento estaban en navarra para que me explicaran

el tema de la unidad móvil nosotros para nada décimos décimos igual sí si nosotros somos mucho más ambiciosos en la enmienda de transacción que ustedes que plantean que esa unidad móvil sea transitoria nosotros décimos hágase un estudio véase cómo se puede aumentar

por las que las mujeres ese diecisiete por ciento que todavía no van al programa vamos a ver cómo podemos incrementar la participación vamos a ver incluso las que van también a la sanidad privada por qué van a la sanidad privada

a aumentar las campañas de sensibilización y concienciación en un tema en el que somos la primera causa de mortalidad entre las mujeres el cáncer de mama vamos a hacer un análisis

y vamos a ver qué medidas se pueden poner encima de la mesa para garantizar esa accesibilidad y esa equidad porque cuando hablamos de accesibilidad

de transacción expresamente la unidad de mamografías pero no lo hemos puesto de forma transitoria como ustedes lo han puesto en su acuerdo de transacción con el partido socialista

ubera tampoco décimos que se estudie ustedes estudian la implantación de la unidad de mamografías en leza pues igual es otra de las posibilidades que hay que poner encima de la mesa pero nosotros

a la iniciativa pero comprenderá que sí me ha sorprendido que a estas alturas de la legislatura y por una cuestión de mera coherencia cuando usted nos dice es que los equipos están estropeados bueno es otra cuestión es una cuestión que si usted tiene constancia de que algún equipo está estropeado

para que inmediatamente los equipos que estén estropeados se repusieran porque eso sí que es un tema grave e importante es decir si usted

equipo está estropeado de cualquier unidad debería de traer una iniciativa

claro como le digo es una cuestión de coherencia es que ustedes han gobernado cuatro años

personalmente con ustedes cuando gobernaron con el señor bengoa y cuando veíamos posibilidades de ampliar el programa de detección precoz de cáncer de mama en euskadi que nosotros planteamos esa rebaja a los cuarenta y cinco años encima de la mesa

nunca nunca nunca se nos puso la alternativa necesaria de una unidad móvil de mamografías nunca y eso que creo que en ese equipo

muy bien la situación de navarra nunca se nos planteó esa propuesta encima de la mesa nunca ustedes la barajaron cuando gobernaron en los cuatro años nunca nos plantearon esa alternativa para mejorar el programa de detección precoz del cáncer de mama en euskadi y más a más ustedes

todos hemos conocido cuáles han sido las enmiendas del partido socialista poquito a poquito hubiéramos podido llegar hubieran ustedes podido llegar a esos cuatrocientos mil euros que vale la unidad móvil y hubiéramos tenido una propuesta concreta

encima de la mesa pero es que ustedes ni siquiera han presentado en estos cuatro años tres años de presupuestos que ha habido una enmienda de estas características y como le digo

rebaja su pretensión inicial porque habla de que sea algo transitorio mientras se arbitran medidas estructurales en los hospitales que tampoco concretan el qué eso sí

de euskadi en los distintos territorios cada una con sus peculiaridades y que se pongan medidas encima de la mesa y entre ellas obviamente cómo no porque

en el resto de comunidades autónomas donde se ha implantado eskerrik asko garrido anderea eh bildutik

por lo tanto roncal anderea preguntaba usted qué hacemos con la población de eibar y de muskiz

puede que sí igual se presta mejor servicio puede que sí

afirmaba que solo hemos llegado al ochenta y uno por ciento le parece poco

la enmienda o el porqué de la enmienda nos hubieran podido explicar ratios de participación

de otras comunidades de otros países etcétera para hacernos una idea más realista de lo que supone

pero bueno en cuanto a los dos años para hacer un estudio señora roncal es que usted misma se mete

no aplicó no aplicó esa enmienda en la que se requería que instalara el banco de leche en el hospital de cruces no lo hizo no lo hizo

no me quiero extender en este tema pero bueno desde luego lo que yo no he dicho es que mil quinientos personas mil quinientos firmas sean poca cosa yo lo que matizado

firmas de algunas mujeres de la rioja alavesa ella ha dicho que eran

quería decir en ningún momento quería decir que pareciera poca cosa

entendemos que el problema de aquí es un tema que tenía que ser netamente sanitario de asistencia sanitario se convierte o se pretende convertir en una especie de arma arrojadiza política para intentar atizar a según que partido una vez le escuché hablar

que hablaba de intereses de algunos y que el partido popular y el pnv tenían

en este tema una vez le escuché al director de un periódico

y últimamente cada vez está quedando más claro que en la comisión de salud tenemos nuestra propia

peticiones sus iniciativas y tiene mucho más de competición propagandística y cada vez está quedando más patente de la existencia de esa uti aurrekontuetan

hace falta un autobús una unidad móvil ya está en toda la comunidad autónoma en cambio en leza hay que hacer un estudio para ver si hay que instalar

en leza sí y en la comunidad autónoma no hay que hacerlo ya lo que décimos nosotros guk hori behintzat ez dugu